aquí es uno que por un lado se está intentando castigar a los mensajeros es decir no el mensaje no lo que es la realidad no los hechos que sí han sido probados decir que estos dos

pero que eran fracasados desde un inicio es decir no contaban con ningún soporte para poder construir sobre ellos un proyecto económico viable

las palabras o las citaciones que se le ha olvidado a usted también citar porque una cosa es que desde la administración pública

y muchas veces publicitarios se puedan poner ciertos proyectos como estratégicos o se quiera vender hacia la opinión pública ciertos proyectos por

van a generar pero que normalmente son y cada uno de esos son auténticos fracasos y por ejemplo en la ciudad de gasteiz a eso estamos acostumbrados y así o con uno de esas grandes palabras fue como

con el tema de betoño son proyectos que no son más que burbuja pero que los utilizan los gobiernos para llegar

estos proyectos es uno el gobierno que los financia

lo que no nos puede negar a otros es que podamos hacer una crítica política a lo que es la gestión de dichos proyectos porque también lo que hay que tener en cuenta y el

más que les pese seguramente están solos no porque algún otro grupo se sienta más cómodo perdón al revés se siente bastante más cómodo algún otro grupo dejándoles a ustedes solos porque si no tendrían que demostrar lo que han estado realizando durante toda la comisión de investigación que es de la mano y eso es así el problema es que en el último momento les vuelven a dejar solos en el último momento tal y como sucedió cuando se pidió

por el voto por la abstención en este caso del partido socialista de euskadi que es quien les obliga a ir a esa comisión y en esa misma comisión mientras les acompaña en todo el discurso

o en determinadas personas en las que no deberían estar confiando sobre todo a la hora de tapar sus vergüenzas habla de la manipulación del informe

y que el resto en un ejemplo de transparencia no hemos

lo que venían a decir aquellas personas que ustedes trajeron claro pero es que hay otro problema de base que es no contábamos con toda la información determinada información incluso ha llegado después de la comisión de investigación de qué estamos hablando me habla usted de transparencias si no se cuenta con toda la información

para sacar la verdad adelante pudiese hacerlo porque es imposible leerse detalladamente

la verdad entender determinados informes jurídicos y que encima se tenga que hacer en un plazo de tiempo que es el que ustedes nos dieron y nos lo dieron pactando con el partido socialista y también

también es imposible que toda la verdad y toda la transparencia de la que usted hace gala pudiese ser puesta encima de la mesa cuando condicionaron

solo podía poner tres personas llamar a la comisión a declarar en el transcurso

que se esclareciese la verdad y sabe por qué porque ustedes no nos dejaron

nula voluntad política ustedes dos no nos dejaron luego también ha hablado que euskal herria bildu pone el problema en el modelo de la evaluación

evalúan dos proyectos al día de centenares de páginas y no solo evalúan sino que analizan y llevan sus conclusiones

para que esos proyectos puedan ser analizados convenientemente porque si una persona realiza dos proyectos al día ya tienen que ser expertos

de algo que en teoría era tan novedoso que nadie sabía hacer pero fueron analizados positivamente

por qué por una razón muy simple porque tenía el impulso político necesario para hacerlo en este país

realmente en proyectos con viabilidad posiblemente estaríamos hablando de que deberíamos contar como mínimo

por lo mínimo no contamos con ninguno y el problema está en que las subvenciones son a fondo perdido

nadie les obliga a devolverlo y eso es así sí eso es así

por qué no se le reclama si no han hecho nada incluso cambiaron aquello que era subvencionable no lo han hecho

usted me da un hecho faltaría más gracias por darme la oportunidad de leer un informe gracias no tengo otra cosa que decirle de verdad y gracias a ese informe pudimos saber muchas cosas gracias se lo agradezco

ha bajado usted aquí yo no sé si bajo con irresponsabilidad pero usted baja con algo que es una soberbia que nos dice además a cada uno lo que está bien y lo que está mal

en su sitio y usted quién es para decirnos a nadie aquí como nos debemos comportar o si nos estamos comportando de una manera u otra usted quién es yo le podría dar mi opinión cada vez que baja usted aquí a qué viene y qué representa

porque no soy nadie para juzgarle qué hace usted y cómo quiere hacer su trabajo parlamentario

nadie pero sí se le puede juzgar por su trabajo y eso es lo que he hecho juzgar que usted fue de la mano del partido nacionalista vasco y usted nos impidió al resto conocer la verdad y hemos dicho en la primera parte de la intervención de lo que estamos aquí

usted es la que marcó hasta dónde podíamos ver porque todo el resto

la relación que existe entre hiriko y el partido nacionalista vasco que es algo que parece que

que no hacemos más que intentar buscar relaciones con el partido nacionalista vasco es que es evidente pero es que es tan evidente que el director financiero de hiriko

el mismo día y cuando euskal herria bildu denuncia y ya ha pedido explicaciones para que vengan a dar aclaraciones al respecto se le cesa pero no se le cesa aparte por incumplir la ley de incompatibilidades

incumple la ley de incompatibilidades porque está en una empresa que casualidad de nuevo casualidad uno de los socios es iñigo antia

es que es decir o el pnv es un partido que tiene más empresas a lo largo del mundo y que no hay posibilidad de caer en una empresa que no sea socio

con el partido nacionalista vasco y es que que usted lo esté negando eso sí que es

falta de transparencia y es que lo que es evidente y lo que se empieza a evidenciar en la relación que tienen determinados partidos con las empresas

a dichas empresas los acaba cobrando

redes clientelares y ese es el problema que existe con las puertas giratorias

de falta de lealtad hacia la ciudadanía para defender el interés público por encima del interés privado eskerrik asko lópez de munain jauna

cuál tiene que ser mi actitud cómo tengo que decir las cosas

tomar mis decisiones arriesgadas de cuál quiero que sea mi actitud y además sí señor maneiro

nosotros hemos admitido la posibilidad de errores siempre que sean demostrables

y reconstruye el texto descubrirá

que así es pero ni las han leído es más las negaron les votaron no en bloque en la comisión y yo que soy muy respetuoso porque nos negaron hasta las de corrección gramatical hoy a la mañana las he retirado porque he

la forma que ustedes querían tener en el texto y por tanto donde tenía que poner comunidad autónoma de euskadi pone comisión europea pues que se quede la comisión europea y donde tiene que poner compra pone compara pues compara porque

las otras cincuenta y tres las mantengo porque son de fondo en el fondo creemos

aún asumiendo todo eso lo único que he venido a decir yo hoy aquí ustedes me pueden decir lo que quieran y cuál tiene que ser la actitud lo único que he venido a decir aquí es que

que era el asesor jurídico del parque que dice qué contrato hay que hacer y que es el que hace el parque ustedes no lo nombran en el informe solo lo cuelgan en el anexo dos informes del tribunal vasco de cuentas públicas dos que dicen que esa operación está bien

y eso significa faltar a la verdad y claro que el parlamento es la política democrática no la verdad democrática

es una verdad lo perdió con la pena general de esta cámara

y ustedes podemos votar pero no lo perdió vale esa es la verdad democrática diferente de la política democrática donde se juntan las opiniones y aquí se ha votado una verdad democrática la suya no la verdad democrática eso para que quede claro porque en el fondo lo que ha funcionado desde el primer momento

upyd eh bildu parece contra natura pero es el que ha funcionado

lo siento lo tengo aquí dentro lo he notado desde el primer momento que vi el primer borrador del informe

hizo lo que tenía que hacer según usted pero es una opinión subjetiva eso puede ser discutible correcto

yo lo único que he dicho es que usted ha puesto en el documento en el informe exactamente lo que dijo unda y no ha citado nada de lo que dijeron otros

que yo lo que quiero es que se ponga lo que dijeron los nuestros para nada yo solo quiero que se ponga la documentación formal con sello que ha llegado

y se valore y cuando el tribunal vasco de cuentas dice que está de acuerdo con una operación que se diga porque le recuerdo su amigo churiaque en el voto particular

y dice que está mal hecha la operación del dos mil nueve en el segundo informe en el primero dice que está bien en el segundo que está mal la del dos mil doce del señor unda también dice que está mal eso no aparece por ningún sitio si es que se juzgan intenciones

está ocultando parte de la información el juicio de intenciones votemos el juicio de intenciones era intención

cuando hay verdades objetivas era intención de la administración ayudar a epsilon

si es una operación regular porque claro aquí se está acusando al valorador de proyectos se le está

porque él mismo contó cuánto tiempo le cuesta en evaluar nosotros no sabemos cuánto tiempo debe costar en evaluar un proyecto de verdad no lo sabemos somos incapaces de tasar

no al técnico que evalúa pero es que el técnico que evalúa en euskadi no sé con cuántas horas toma una misma decisión y le valora exactamente igual en puntos

en un sistema concursal porque claro aquí lo mismo señor barrio le echamos en cara la responsabilidad política al consejo de promoción económica

en qué quedamos el consejo vale o no vale miren

como por ejemplo cuando eh bildu acusa a tokiko
de tener a toda la gente otra vez del pnv isiltasuna

tiene un sistema dialéctico alucinante pero bueno

y uno de los de tokiko fue candidato al senado por eh bildu

los otros no son del pnv otra cosa es que puedan oler al pnv porque a ustedes les huele todo ahora si porque alguien vote al pnv ya es

cientos de miles de vascos están condenados ya por ustedes previamente para no recibir ni una ayuda ni siquiera un golpe amistoso del gobierno y yo no voy no me gustan estas cosas son más propias de la bancada de la izquierda pero son malas fotos pero

el señor maroto el señor de andres el señor basagoiti la señora garrido visitando cariñosamente

el señor maroto el señor de andrés con el coche hiriko en bruselas

sentados en el hiriko y es el pnv el culpable político

bien yo en cualquier caso no puedo terminar no puedo terminar sin unas frases claro yo tengo que regalar a esta cámara unas frases

especialmente nefasto para la verdad he dedicado una a cado uno de los grupos

cuando estaba en pleno proceso de reconstrucción teórica del materialismo dialéctico entre tantas cosas dijo

la redención discursiva de una pretensión de verdad lleva a la aceptabilidad racional no a la verdad

se puede pecar contra la verdad lo mismo por omisiones calculadas como por informaciones inexactas pecar

es el hombre el que hace grande a la verdad y no la verdad la que hace grande al hombre

y el gran chavez don hugo tras mirar sus discursos dale que te pego solo encontré una apelación a la verdad cuando dirigiéndose a la

señora presidenta ha dicho usted una gran verdad hay que almorzar y le diré les diré

que han hecho lo contrario de lo que propugnaba el sabio y nunca bien ponderado séneca que dijo aquello de prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones hoy aquí se ha adulado para complacer y sumar y el único que se ha comprometido a decir verdad para molestar

porque en resumen el informe que van a aprobar miente es mentira que oculta verdades comprobables que cambian en relato si creen por cierto que es una acusación falsa

gracias presidenta tomada ya en consideración esta proposición de ley y más allá de nuestra abstención tenemos que decir que estamos básicamente de acuerdo con lo fundamental que se propone en esta proposición de ley en todo caso y sobre todo estamos de acuerdo y nos parece bien que se abra el debate sobre lo que se propone y estamos de acuerdo con que

todos sobre todas estas cuestiones que se citan en la proposición de ley de hecho ya hace aproximadamente dos años y medio esto mismo defendimos en el congreso de los diputados cuando votamos a favor de una proposición de ley de izquierda unida que pretendía regular

legal de la eutanasia debate donde por cierto el partido popular y el partido socialista votaron en contra a nosotros nos parecía bien

de ley de izquierda unida y en aquel debate decíamos exactamente lo siguiente la sociedad española merece un debate sosegado

sobre un tema que ya está ocurriendo y no por dejar de hablar de ello va a desaparecer y más recientemente hace menos de un año aprobábamos en nuestro segundo congreso la siguiente resolución política proponemos avanzar en la regulación legal del derecho a la muerte digna es decir a disponer

de la propia vida sin sufrimiento adicional o eutanasia en situaciones donde la persona interesada plenamente consciente e informada no puede decidir y actuar por sí misma a consecuencia de cualquier impedimento físico necesitando del auxilio de profesionales de la salud para dar fin a un sufrimiento insoportable la regulación de este derecho deberá tener en cuenta la máxima protección jurídica del solicitante

a auxiliarle sobre la base de que la solicitud debe ser expresa y reiterada con plena información y conciencia del afectado y del profesional sanitario

upyd defiende sobre la cuestión en conclusión nos parece un debate muy interesante y muy necesario participaremos en la ponencia y

gracias señora presidenta con brevedad aprobada la iniciativa la toma en consideración desde luego mi grupo

elaboración de las enmiendas y en lo que sea la ponencia que se constituya

el debate puede ser interesante y puede haber un planteamiento que sin duda será constructivo pero para nosotros no era una prioridad ahora la cámara tiene una actividad muy intensa se anuncian diez proyectos de ley inminentes bueno y vemos que al final lo que busca esta

no hay una inseguridad jurídica efectivamente podemos perfeccionar seguramente y se podrá hablar pero no hay una necesidad una perentoriedad en estas cuestiones porque hay que reconocer que lo que se trata de regular ya está regulado la ley cuarenta y uno barra dos mil dos de autonomía del paciente en euskadi la carta de derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del servicio vasco de salud por diferentes decretos

la ley de calidad del sistema nacional de salud la ley siete barra dos mil dos de voluntades anticipadas

la estrategia de cuidados paliativos el decreto del comité ética asistencial

estos derechos ya están plenamente garantizados por la ley y por la diferente normativa pensamos en principio independientemente de que siempre se puede perfeccionar y profundizar además de los códigos deontológicos

claves y las pautas que coinciden y que van en paralelo con la normativa o sea que

que la cuestión ahí está y que no era una prioridad

para tratar de mejorarla porque es muy mejorable porque hay un alto nivel de confusión jurídica también un planteamiento ético

hay alguna discrepancia desde luego en relación con la cuestión de fondo que se nos plantea pero en fin lo trataremos de solventar vuelvo a decir de cuestiones

tan necesario abordar ahora de una manera prioritaria

he visto los debates de navarra en andalucía en aragón donde ha habido leyes de estas características y todos han dicho lo mismo los debates era una cuestión que ya estaba regulada vamos a hablar vamos a concretar vamos a clarificar alguna cuestión

de cuestiones lo he planteado en relación con lo que puede ser una prioridad vuelvo a decir

en cualquier caso señorías participaremos de

en la elaboración del texto definitivo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

no sabemos ni cuándo ni cómo pero lo cierto es que lo dijo borges la vida

es explicar el voto favorable de los socialistas vascos

un consenso unánime ya partimos de algo unánime y consensuado en la idea en el deseo de que las personas merecen vivir y por lo tanto morir dignamente es lo último que hacemos en nuestra vida el actofinal y por eso una vida digna exige

pero el consenso unánime en puridad señorías se da solo hasta aquí porque en este asunto en el que convergen filosofía ética medicina

y creencias todos absolutamente todos tenemos nuestros propios planteamientos nuestra propia filosofía filosofía de vida y filosofía de actitud

obviamente no tenemos ni tendremos jamás experiencia eso va de suyo pero hemos visto morir a nuestras

y en la medida de la conciencia de nuestra propia provisionalidad cada quien y cada cual sabe más o menos cómo quiere que sea

por ejemplo el derecho de poder decidir el cómo y el cuándo y que el objetivo no es otro que proteger la dignidad de la persona en el proceso final de su vida asegurar su autonomía

ahora bien señorías es cierto que tendremos mayores problemas que se plantearán respecto de la posibilidad o no de exigir de otros que se materialice ese cómo y ese cuándo teniendo por ejemplo en cuenta que actualmente el código penal tipifica como delito

asistido de modo y manera que será aquí en esa sede de establecer cómo y cuándo si ayudados de terceros donde habrá que argumentar donde deberemos argumentar

desde el punto de vista tanto ético como moral como jurídico y utilizar

los mejores mimbres para garantizar lo que las personas reclaman en el momento final de su vida aunque es cierto efectivamente

sí es cierto que con los medios técnicos que tenemos con los servicios

médicos que tenemos sí estamos en condiciones de garantizar eso que también se ha dado en llamar una buena muerte pero como decía antes cuando hablaba del consenso unánime sobre la idea del derecho ético

señor barrio y a pesar de la existencia de numeroso

la dignidad de las personas enfermas no existe desde el punto de vista puramente técnico jurídico ni político ese derecho en sentido estricto por eso el partido socialista quiere introducir

en la constitución y en sede de derechos fundamentales porque lo que se trata es de reconocer y poner negro sobre blanco lo que las personas

interiorizado como propio porque en este asunto señorías y lamentablemente igual que en otros la política no ha avanzado al ritmo de los pasos de la sociedad

los criterios y condiciones que el sistema sanitario deberá desarrollar para garantizar una atención adecuada durante el proceso final de la vida basada en evitar el sufrimiento el objetivo debe ser proteger

asegurar su autonomía en la toma de las decisiones y el respeto absoluto a su voluntad señorías esta proposición de ley abre una oportunidad inmejorable a un debate necesario que propiciará o por lo menos así lo deseamos los socialistas vascos

y libertades fundamentales de las personas el ordenamiento jurídico está llamado a concretar y proteger el ideal

digna y es labor de la política es labor de la política encontrar el máximo consenso para elaborar una ley que nos garantice que vamos a afrontar de la mejor manera posible el ciclo terminal de nuestras vidas señorías eso es el

porque seguro que la garantía de morir bien hará que podamos vivir mejor salud

cámara se sustanció en este pleno una interpelación

de cultura oímos y hablamos sobre esta cuestión sobre la feria del libro y disco vasco

y sobre su preservación y sobre sus problemas y sobre qué poder hacer para mantener la calidad y el éxito cultural de la feria

el pasado mes de junio producida también esa comparecencia en comisión de cultura de los representantes de la asociación gerediaga

de la feria del libro y disco vasco de durango también el pasado nueve de junio nos encontramos con que era

una moción después de esa interpelación en el sentido que ahora debatimos es decir por un lado para garantizar el buen funcionamiento y el éxito cultural de la

durango de la citada feria y también de cara al futuro para profundizar en su plasmación presupuestaria para próximos ejercicios especialmente

que coincide con el cincuenta aniversario de la organización de la azoka bueno aquí estuvieron

asociación gerediaga y nos dijeron nos explicaron los problemas las dificultades que se encuentra en este momento la organización de la feria

fundamentalmente por las necesidades de financiación vinieron aquí el nueve de junio también han pasado cosas desde entonces

entendemos que se hace necesaria una mayor aportación económica para realizar y mantener con solvencia

vuelvo a decir de calidad cultural editorial musical de primera línea la feria se mueve en dos ámbitos el espacio de la creación en euskera básicamente

definida esta en euskera y también en castellano

nosotros entendemos debe de ser preservado debe de ser respaldado la feria de durango en el siglo veintiuno debe de acomodarse

con uno u otro estilo sin complejos sin limitaciones por eso es bueno también que con el departamento

también de una de sus expresiones en este caso esta feria de sus expresiones más características en relación con la promoción con la difusión de esa cultura y de entender que hay que trabajar entre todos por preservar su éxito por preservar su andadura como decía antes los organizadores de la

del libro y disco vasco más importante han alertado de nuevos recortes en su momento de una situación económica de ayudas que recibían en este momento hay una situación un tanto insostenible efectivamente

indicaban que la situación era comprometida complicada dieron cifras dieron datos todos están

recordaron la importancia de esa feria que reúne ellos hablaron de

presentado y nos han presentado a los grupos parlamentarios su carácter estratégico sus planes estratégicos

además de vertebrador también y vertebradora la feria de creación vinculada íntimamente estrechamente

bueno la verdad es que hemos conocido también alguna intención del gobierno vasco última de incrementar de hacer una revisión en el planteamiento de incrementar alguna ayuda volvemos a decir que ellos nos dijeron los organizadores de la feria que solicitaron al gobierno vasco que destine ciento cincuenta mil euros el gobierno vasco parece que destina

nos pidieron a la comisión también ese compromiso de profundizar y avanzar para próximos años en esa aportación económica y eso estamos haciendo eso estamos haciendo ese análisis también lógicamente la asociación los organizadores

hablar con otras instituciones u otros ámbitos culturales está bien claro que aquí el trípode

la importancia en la vinculación financiera económica con esta feria pues es el gobierno vasco es la diputación foral de bizkaia y

hay que abrir también se puede abrir ese abanico pero en cualquier caso ahí está el trípode y nosotros estamosen el parlamento vasco

al gobierno vasco su implicación más directa nuestra moción hablaba de que el gobierno vasco incremente la aportación para este año

considere la importancia cultural y garantice el mantenimiento de su nivel y la participación del sector en relación con esta cuestión vale es una moción que insta al gobierno a que

analice esa situación de dificultad que está pasando la feria y que

eskerrik asko presidente andrea hablamos de la feria de durango durangoko y hablamos entonces de un asunto que a mí me importa afirmar que es

para la cultura vasca actualmente y fundamentalmente para la cultura que se hace en euskera

audiovisual en sentido amplio es una feria con una gran tradición va a hacer cincuenta años los que solemos

visitarla sabemos de la afluencia de público esos cien mil visitantes que además

parecen más y sobre todo algo que nos debe importar aquí es que es un escaparate fundamental para la industria editorial y para la audiovisual es sobre todo y ante todo una feria profesional de un elemento fundamental de la cultura vasca que es la producción editorial tanto castellano como en euskera de eso hablaremos un poco más adelante fundamentalmente

para la promoción del euskera estos elementos configuran un escenario de feria actuación que creo que hay que proteger que hay que ayudar a que sobreviva podremos revisar con ellos el modelo podrá el gobierno vasco analizar

pero tenemos que entre todos lograr que un evento tan importante siga adelante y para eso se necesita financiación

en la comparecencia que hicieron aquí en el parlamento han ido tirando

no hay más caja de donde tirar y necesitan un dinero para tener una sostenibilidad en su funcionamiento estimaban que ahora mismo la necesidad acuciante es de seiscientos mil euros

que las administraciones públicas en su conjunto

de la financiación el resto o va a déficit puede ir a déficit lo que no cubren los ingresos privados por la actividad

y cuestiones de ese tipo claro las administraciones públicas digo están obligadas a acudir a la ayuda de una feria que

una feria profesional es fundamental pero además

para la cultura vasca y específicamente para el euskera por lo tanto al ser algo que engloba todos estos elementos entendemos que el principal responsable es el gobierno vasco es decir no parece que tenga que ser a partes iguales la financiación de las administraciones puesto que no todas tienen la misma responsabilidad en la promoción de la cultura

de ámbito global corresponde sobre todo al gobierno vasco corresponde también a las diputaciones forales porque algo de promoción cultural hacen porque la feria está

ubicada en bizkaia por lo tanto tiene una responsabilidad especial la diputación foral

pero las empresas editoriales y audiovisuales vascas producen en gipuzkoa producen

también deben de acudir porque toda la industria vasca está repartida por el territorio aunque de manera desigual y finalmente el ayuntamiento de durango por razones obvias porque es donde se ubica

hay elementos suficientes para en una mesa el gobierno vasco las administraciones públicas sentarse y hacer

aportaciones teniendo en cuenta que haya sostenibilidad en el tránsito de la feria y sobre todo también lo que

en las condiciones más adecuadas pero siempre con el norte de que debe seguir adelante por eso la transacción que agradezco a la señora breñas que además

a pesar de que nuestras iniciativas diferían en bastantes puntos porque nos hemos encontrado en el interés ahora mismo inmediato de que la feria siga adelante y que se arme una estructura de financiación de futuro que lo armen las administraciones a parte de los ingresos privados que tiene que obtener lógicamente que permita su

lamento que tendremos que votar en contra de su propuesta

y para que salga la nuestra que es más completa entiendo

a cantidades concretas porque es lo que urge establecer un mínimo del que no está tan lejos el gobierno vasco porque este año creo que ha

con lo cual no estaríamos tan lejos en el segundo punto de la transaccional se pide precisamente que las instituciones concernidas a las que me he referido establezcan la estructura de financiación de mutuo acuerdo y que además todo esto se haga con una

y eso porque da garantías a esa continuidad no es participar en el concurso queda por lo tanto por comentar

vasco del señor arieta araunabeña con la cual no podemos compartir dos elementos principales uno de ellos es que

se refiere a una estrategia nacional incluir a las instituciones navarras en el proceso de financiación claro a nosotros nos parece que lo que importa es la feria y que luego

en el sentido político del término no es lo que debiera incidir ahora en buscar una solución para una feria en la que nos encontramos todos

y porque trata de cultura vasca además nos parece que no es adecuado ni técnicamente porque qué ocurre con las empresas editoriales que van a madrid a una feria o van a frankfurt a exponer

qué subvención tiene que dar a esas ferias es lo mismo porque navarra no está gobernada por este gobierno ni por este parlamento

va a tener que el gobierno vasco negociar con el gobierno

españa o sea de alemania lo que tiene que este gobierno vasco aportar no lógicamente se hace lo que se ha hecho siempre

se dan ayudas a las empresas cuando salen fuera del ámbito de euskadi para que ocurran a una empresa profesional mucho más sencillo y mucho más

una propuesta políticamente radical o de radicalidad política tampoco compartimos que

de que la cuantía sea semejante entre las diputaciones y el gobierno vasco por lo que he dicho antes la responsabilidad no es la misma por

no es la misma en todas las instituciones y para acabar sí quiero decir que esta feria que defendemos si es de euskera

que es de la cultura vasca entonces nosotros creemos que tiene que incluir sin restricciones la producción en castellano y en euskera

que incluye pero parcialmente es decir incluye un libro si se ha escrito en euskera y luego se ha traducido al castellano

a la feria de durango aunque es la feria de las empresas vascas relacionadas con la cultura vasca cultura vasca es la que hacemos los vascos en este caso que es profesional la que producen

vascas en cualquiera de nuestros dos idiomas euskera o castellano y si no tendría que ser únicamente de euskera por eso que no es el objeto de hoy que es la financiación que siga la feria este grupo el grupo socialista

aurten erabakitzea zeinek izango diren dirulaguntzak en este sentido manifestó que pedían a todas las instituciones

y que aumentasen sus aportaciones con especial referencia a la diputación foral de araba por la grave situación que atraviesan debido a una falta absoluta de relaciones

algo que el gobierno y ya lo digo se compromete a hacer no da ninguna vuelta sobre la financiación señora breñas honen aurrean

ez dute euro bat gehiago ere ipini nahi qué hacen los distintos grupos ante esta situación euzko abertzaleak

pero no se plantea pedir a la diputación foral de álava no ya que atienda a la petición de gerediaga

actuales además pone el énfasis en la potenciación de la cultura

el grupo socialista se limita a una enmienda en la que no concreta nada algo entendible por la respuesta recibida de gerediaga sobre la potenciación de la cultura en castellano que este grupo ponía como condición para su apoyo euskal herria bildu

haga una aportación superior incluso a la solicitada por gerediaga para esconder que la diputación foral de gipuzkoa no va a atender a la petición de aumento de financiación

esto lo dice en el punto primero de su enmienda no acepta el debate conjunto

y las instituciones respecto al modelo exigiendo que no se toque el actual proyecto punto dos de su enmienda solo parece aceptar el diálogo

punto cuatro de su enmienda aunque esto en realidad no es más que mera pose puesto que en la propia enmienda ya ha decidido las cantidades que tiene que poner el gobierno y cada una de las instituciones

en los puntos uno dos y cuatro de dicha enmienda se deja claro

en función de la ubicación sin tener en cuenta a los creadores productores

en el punto cuatro de la enmienda están haciendo algo que ya rechazó explícitamente gerediaga en su comparecencia donde explicó con detalle los beneficios de la azoka para todo el país y su carácter nacional es de resaltar que en dicha graduación

y hete aquí que no aumenta siquiera en toda la relación al gobierno de nafarroa excluyéndolo del ámbito nacional algo que queda corroborado en el punto quinto de su enmienda cuando

una negociación con el gobierno de navarra en vez de pedir directamente dicha implicación y llevar la petición directamente a las instituciones de nafarroa mediante su grupo

es que acaso no hay cultura vasca en euskera en nafarroa que vaya a la durangoko azoka y esto vale exactamente igual para usted señor reyes en este mismo punto cinco se dice

es la principal referencia de la cultura en euskera aunque mejor

pero todo esto si era ya poco valía antes de la transacción firmada con el grupo socialista que como hemos dicho ponía como condición para su apoyo la potenciación de la cultura en castellano algo que gerediaga se negó

de la feria profesional en euskera y castellano pero lo dijo así en la transacción firmada desaparece toda mención a la azoka como proyecto estratégico nacional desaparece toda referencia a la cultura en euskera y por supuesto cualquier referencia a nafarroa todo ello como condición impuesta por el grupo socialista para su firma

sí gracias presidenta yo pensaba que este asunto estaba ya zanjado pero

y observo además que en la política vasca se abren nuevos horizontes y nuevos posibles acuerdos incluso sobre cultura vasca entre grupos políticos supuestamente antagónicos y al parecer vamos a

y voto favorable de una iniciativa sobre la cultura vasca eh bildu el partido socialista de euskadi y el partido popular y todo esto porque el señor barrio ha considerado que este tema no está zanjado

traerlo a debate a este pleno y porque ha considerado incluso tal y como nos ha anunciado la portavoz del grupo de eh bildu que incluso el partido popular votará de esta iniciativa ya digo que yo pensaba que el asunto estaba ya zanjado visto lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses pero parece que no

de este parlamento hable a primeros de octubre sobre la financiación de la feria de durango para los próximos dos años en fin cada uno sabrá qué prioridades políticas tiene y hacía dónde camina

a comienzos del mes de junio comparecen en sede parlamentaria los responsables de la azoka para decir que no pueden mantener el actual modelo de feria con las subvenciones que tienen actualmente y que arrastran un déficit de más de cincuenta mil euros al principio el gobierno

salirse por la tangente diciendo que se tienen que implicar más instituciones lo cual puede ser entendido como algo razonable y que no solo el gobierno tiene que correr con la mayor parte de las subvenciones pocos días después el gobierno decide subir dos veces la subvención inicial hasta llegar a los ciento veinte mil euros según los datos de los que un servidor dispone finalmente

organizadores en fin se da por satisfecha con este

que ahí había terminado el debate y la cuestión pero ahora tenemos la moción planteada por el grupo popular y las enmiendas del resto de grupos que pretenden básicamente un incremento presupuestario para este evento

nosotros pensamos que antes de hablar de incrementos presupuestarios bien provengan estos incrementos presupuestarios del propio gobierno o de las distintas diputaciones forales o del ayuntamiento de durango yo creo que es interesante sobre el modelo de feria que queremos tanto el grupo nacionalistas vascos en su enmienda como el señor reyes en su discurso han apuntado hacía este asunto hacía la necesidad estudiar y observar el modelo de feria que tenemos entiendo yo que para analizar si efectivamente funciona correctamente

el modelo de feria que tenemos para a partir de ahí decidir incrementos presupuestarios o no y no al revés

nosotros vamos a votar en contra de la moción y en contra de las distintas enmiendas también la transaccional que se han presentado porque pensamos que es fundamental el modelo por ejemplo habría que decirles a los promotores y subvencionadores de este evento que sería conveniente que fuera realmente una feria de la cultura vasca

en el que se produzca fundamental en nuestra opinión la cultura vasca es la cultura que se hace en euskera y también la que se hace

es decir sin la utilización de ninguno de los dos idiomas oficiales esto es cultura vasca y por lo tanto hay que analizar el modelo actual de feria

modelo de feria no respeta este principio básico que upyd defiende y que hasta hoy

pensábamos que compartíamos con el grupo popular al menos y quizás también

vamos a votar en contra de todas sus iniciativas también de la enmienda planteada por el grupo nacionalistas vascos porque insta al gobierno de navarra cuya política cultural y subvencional entendemos que debería ser autónoma y

de la que se pueda realizar en euskadi por eso votamos en contra de todas las iniciativas en contra también de la transaccional firmada

apoyará en fin las cosas están cambiando en euskadi y algunas a peor el partido popular

y eh bildu unidos en una iniciativa sobre la cultura vasca el partido popular y el partido socialista de euskadi están

del señor maneiro nosotros lo tenemos muy claro señor maneiro lo tenemos muy claro nosotros no somos

somos foralistas señor maneiro usted lo sabe bien y precisamente coincidimos en algunas cuestiones pero hay una clave

y seguimos convencidos nosotros somos foralistas y la cultura vasca

de esa forma de entender el país vasco que tenemos los foralistas álava

gipuzkoa los fueros las instituciones forales y la cultura vasca eso lo tenemos muy claro señor maneiro siempre vamos a estar en la vanguardia no vea usted

con normalidad y naturalidad cómo gracias al partido popular

del departamento de cultura se ha incrementado las partidas para euskaltzaindia hemos defendido cantidad de cuestiones que tienen que ver con este tema

ese sentido no se tenía que sorprender bueno no se sorprende lo trae

cuáles son esas características que tenemos nosotros en relación con lo que se presenta pues la enmienda del partido nacionalista vasco

lógicamente el andar instando desde parlamento vasco a otros gobiernos de otras comunidades autónomas lo vemos extemporáneo no forma parte de la idoneidad de lo que tiene que ser un pronunciamiento de este parlamento que se tiene que concentrar fundamentalmente en el gobierno vasco que es lo que hemos

desde luego es lo que queríamos señor arieta

se ha hablado de la azoka de sus problemas de la necesidad de potenciarla de apoyarla ha tenido problemas o vicisitudes

igual ellos verán por dónde van pero igual por minimizar

igual tienen parte de los problemas igual sea por eso igual sus planes estratégicos tienen que estar en ser más ambiciosos en abordar de una manera más integral

decididamente y en ese sentido pues nosotros les ayudaremos

ir por ahí y desde luego que estaremos pendientes y atentos de lo que

y desde luego en relación con otras instituciones estamos en el parlamento vasco controlamos al gobierno vasco entendemos y lo he dicho al principio que esto forma parte de un gran trípode

el gobierno vasco la diputación foral de bizkaia

hay que hablar hay que coordinar pero porque al fin y al cabo estamos hablando de algo que objetivamente puede beneficiar a todos pero fundamentalmente beneficia a bizkaia por muchas razones económicas

yo creo que lo demás vamos a analizarlo con normalidad que los demás hagan lo que puedan y desde luego vamos a instarles también a que hagan un esfuerzo pero el que nosotros exigimos a día de hoy

estamos en el parlamento vasco y en ese sentido ahí nos movemos

señor maneiro ese vasco escepticismo que le acompaña últimamente

señor barrio y cariñoso además pero le aseguro que cuando estaba escuchando

contencioso que se tiene con el pnv me ha sonado inconscientemente de verdad a eso de jaungoikoa eta lege zaharra y bueno desde una clasificación política

muy distante respecto a lo que estamos hablando de todas formas

señora breñas no es mi ánimo hoy discutir ya digo que anuncio que

pero sí he querido puntualizar nuestra postura respecto a la feria y quiero

en la feria de durango porque solo se admiten no los que están escritos originalmente en castellano sino los que son traducción del euskera o hablan de temas vascos

ir por ejemplo es decir tiene que tener dos características o una temática relacionada con asuntos vascos

al castellano si no no puede o sí se excluye pero bien y aún así eso es algo que yo discutir en esta cámara porque me parece que se está desenfocando no sé si consciente o inconscientemente el asunto

no es esa la cuestión es que la feria dice que es una feria profesional de la cultura vasca y entonces no vale decir que es que no queremos

gobernando departamentos que han hecho promoción del euskera y apoyando siempre los presupuestos idealécticamente el euskera eso

porque los hechos son los contrarios y yo creo que debemos de todos buscar

y todos sigamos promocionando el euskera los socialistas en primera línea como hasta ahora

que la feria es de cultura vasca y cultura vasca es la que se hace en nuestros dos idiomas oficiales en euskera y en castellano

no diría nada o podría razonar que se ampliara pero es que no es cultura hecha en euskera es cultura vasca y cultura vasca yo no sé si ustedes

lo relacionan con cultura en euskera pero no es cultura vasca es la que se hace en los dos idiomas oficiales incluso yo no tengo ningún inconveniente en que un vasco lo haga en inglés en brasil me da igual

es amplia es universal no tiene que cerrar los campos y mucho menos negar la realidad en la que florece y la realidad en la que florece

que tenemos que potenciar más porque está en una situación peor

la promoción del euskera las medidas a favor de la producción del euskera con que

porque vascos son los dos eso es lo que quería aclarar

estaríamos hablando en euskera si llamo de cultura vasca estamos hablando de los dos

ez hori bakarrik dio durante el encuentro mantenido ayer también se acordó que gerediaga solicite a otras instituciones que se implique a la financiación de la azoka ya que el euskera y la cultura en euskera no nos concierne solo al gobierno vasco

entre las instituciones que serán llamadas para que se involucren económicamente en esta importante cita cultural se encuentran las otras dos diputaciones gipuzkoa y araba el gobierno foral de nafarroa y el ayuntamiento de durango beraz hemen jarraitzen dugu

ez zuena organizazioak eskatutakoa es falso que los promotores dijeron que con que el gobierno ponga ciento setenta mil euros pueden afrontar su quincuagesimo aniversario

literalmente dijeron que de las decisiones que se tomen este año por todos nosotros

lo que sucede es que no quieren que las instituciones donde ustedes gobiernan hagan mayores aportaciones que las que hasta ahora han estado realizando comparen estas cosas con las iniciativas que han presentado tanto el partido popular como eh bildu esta es la importancia real que le dan ustedes a la azoka

de la cultura en castellano dentro de la azoka tal y como manifestó el señor reyes en la comparecencia de junio

que el euskera tiene un presupuesto excesivo y pide la retirada de la agenda estratégica del euskera y hoy pide al gobierno vasco más financiación para un proyecto estratégico de la cultura en euskera aunque como he sabido lo hace para que la diputación foral de araba no aporte más de los dos mil euros y de paso despistar a los miles y miles de participantes

eta instituzioen arteko elkarrizketari nosotros también podríamos haber firmado una transacción ya que como he dicho el gobierno esta dispuesto a poner ciento cincuenta mil euros para el dos mil quince pero firmar a costa de qué

no a costa de retirar que su objetivo es la cultura en euskera no a costa de retirar

hay y se hace cultura en euskera no a costa de negar el diálogo entre las instituciones y la azoka sobre el modelo de la misma y no a costa de retirar la petición

tal y como nos pidieron los representantes de gerediaga elkartea

buen intento señora breñas para tapar en su segunda intervención lo que ha firmado

del castellano en la azoka de durango del partido socialista el partido popular hombre no nos intente hacer comulgar con ruedas de molino por favor

no quiere implicarse de verdad en un proyecto estratégico de ámbito nacional para la cultura en euskera no vengan en adelante a dar lecciones sobre la construcción nacional el euskera o la colaboración entre las instituciones y los agentes sociales pues no tienen credibilidad después de lo que han hecho hoy aquí no tienen credibilidad en esos ámbitos

solamente insisto se deja engañar quien quiera dejarse engañar mire con respecto al tema de nafarroa que

puesto encima de la mesa el partido socialista el partido popular y upyd para no apoyar nuestra transacción qué pasa que no hay productores industrias creadores

que sean de nafarroa que hagan cultura en euskera se les niega acaso la presencia

en la azoka de durango incluso hasta a los que llevan también sus producciones en castellano no verdad pero qué pasa no participa el gobierno de nafarroa con ayudas al euskera en otros ámbitos verdad que sí a todos nos vendrá enseguida

alguna de las instituciones más importantes de este país a la cabeza entonces por qué no en este ámbito que también es tan importante y que tiene tanta participación de la sociedad navarra